gracias señora presidenta ya buenas tardes casi a todos bien como ya se ha dicho aquí

la iniciativa tiene dos propósitos que ninguno de los dos y los dos se han debatido en esta cámara por una parte está

y por otra parte estaría la de tratar de reincorporar al mercado laboral a los parados de larga duración y especialmente en el sector de la construcción

en primer lugar y con relación al primer objetivo ya lo hemos dicho otras veces en esta cámara

también se pone de manifiesto en la iniciativa

más viejos de europa de este parque de viviendas más del treinta por ciento tiene más de cincuenta años y casi el cuarenta por ciento entre treinta y cincuenta años

que dicho parque necesita obras de rehabilitación y entre las que son muy importantes y en esta cámara precisamente este grupo parlamentario presentó una iniciativa al respecto

según el eustat en el año dos mil diez el treinta y cuatro por ciento de los edificios en euskadi todavía no tenían convenientemente resuelto la accesibilidad a la vivienda y al resto de espacios privativos del inmueble

emitiese una recomendación la dos barra dos mil trece de fecha de cinco de febrero que dio lugar a una iniciativa presentada por este grupo y que precisamente lo que ponía de manifiesto era esa necesidad de garantizar la accesibilidad a aquellos edificios residenciales colectivos

y una de las fórmulas era precisamente la instalación de ascensores para que muchas personas mayores no tuvieran que verse obligadas a vivir confinadas o aisladas

físicos que son insalvables para aquellos cuya movilidad está reducida por cualquier causa

y también en aquello que tiene que ver con la regeneración de los espacios y adaptación de los espacios urbanos

administraciones es verdad que es necesario que todas las administraciones públicas atiendan de forma prioritaria a la rehabilitación del patrimonio residencial atendiendo sobre todo a criterios de accesibilidad pero también de sostenibilidad y de ahorro energético todas las administraciones siempre dentro de sus respectivas competencias y como se ha dicho aquí en el propio plan

en impulsar un nuevo modelo de rehabilitación sostenible e integrador y en ese plan y dentro de numerosos planes

para que la dificultades económicas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo

esas dificultades es para lo que se han ido concediendo esas ayudas a la rehabilitación el gobierno vasco como el gobierno central u otros gobiernos autonómicos

renove como he dicho anteriormente que tenemos en el gobierno vasco y este programa ha sido efectivo y a través

se han dado forma a este tipo de iniciativas también en otras administraciones como ayuntamientos se disponen de partidas para conseguir estos objetivos

que si se coordina que si se va en paralelo las distintas administraciones y coordinan sus programas y sus recursos se lograría mayor eficiencia y eficacia

en pie de igualdad porque como se ha dicho aquí no coordinar desde el gobierno vasco porque eso competencialmente no es posible yo comprendo que ustedes señores socialistas

la propuesta que tuvimos ocasión de debatir la semana pasada en el que pretenden que todo se centralice desde el gobierno vasco y que sea el gobierno vasco

aparezca como el motor de las actuaciones de todas las administraciones pero hay que respetar la competencia y la autonomía de todas las administraciones ayuntamientos incluidos y en segundo lugar como también se ha dicho aquí

que es que a través de esta rehabilitación y regeneración de espacios urbanos además de conseguir entornos y edificios más accesibles se pueda volver a incorporar al mercado laboral

a una serie de personas quizás de los más afectados

una mejora en las cifras de empleo de este colectivo en euskadi

son muy abultadas porque han sido uno de los colectivos

y así en euskadi un setenta por ciento de los parados se consideran parados de larga duración y en este sentido también desde otras administraciones

se ha puesto el objetivo en ellos y por ejemplo en los presupuestos generales del estado del año dos mil dieciséis

este plan de orientación laboral para beneficiar a los parados de larga duración entre treinta y cincuenta años y

y especialmente dentro de estos parados de larga duración están como se ha dicho aquí los parados procedentes de la construcción que es uno de los sectores que ha sufrido como poco

y cuya reincorporación al mundo laboral ofrece más dificultades es verdad como también ha dicho el señor aldaiturriaga que es un sector que se está recuperando hoy mismo lo hemos visto

de desempleo proceden de ese sector y así por ejemplo en octubre fue uno de los sectores que disminuyeron

pero claro debe de ser un instrumento que funcione lo que no se pueden hacer es cantos al sol que luego realmente no funcionen porque se ha dicho aquí si usted dice que se haga un plan integral de regeneración de viviendas quién es el que se va a poner a regenerar las viviendas

va a ser el particular porque claro si va a ser el particular será el particular el que con ayudas de la administración efectivamente pero será el particular el que contrate o la comunidad de propietarios

empresa que considere más pertinente y más conveniente cómo va usted a conseguir que ese particular cuando regenere su vivienda

contrate a una empresa que a su vez haya contratado a parados de larga duración

salvo que lo que venga a decir es que directamente desde la administración es decir gobierno vasco o ayuntamiento se hagan esas obras de rehabilitación en las viviendas salvo que sea así otra cosa es en la regeneración de los espacios públicos de los ayuntamientos pero que sean los ayuntamientos los que en su caso se pueden

de directrices para que eso se haga así y luego otra cosa que le quería decir es que usted aquí la semana pasada sin ir más lejos

no lo ha dicho solo la semana pasada lo ha dicho más veces a propósito

que no le pusiera más deberes al gobierno que además para qué le iba a poner más deberes al gobierno si no los iba a cumplir y yo lo que le digo

a ustedes les van a hacer más caso que al resto pero al margen de eso le pongan o no le pongan deberes ustedes tienen una

en su mano para conseguir que si lo que se quiere es que haya planes de formación específicos para parados de larga duración que incorporen a personas

que la rehabilitación de viviendas y la regeneración de espacios urbanos sea más intensa de lo que es en este momento incluyan partidas en los presupuestos del dos mil dieciséis enmiéndelas

podrán conseguir ese doble objetivo una mayor regeneración una mayor rehabilitación y una mayor ampliación de los programas de empleo

no ha sido en ningún caso la intención si así lo parecía

lo que pasa es que la innovación normalmente consiste justamente en aprovechar el conocimiento ya reunido es decir la innovación no se hace sobre un conocimiento

acciones que se vienen haciendo nosotros no hemos negado esa realidad y lo que décimos es que sabiendo que todos esos programas

hablábamos de conectarlos de trenzarlos con el entramado institucional claro han surgido cuestiones sobre la naturaleza de la coordinación bueno hay un deber genérico de las administraciones de cooperar entre sí cierto entonces nosotros le damos ese significado a la coordinación porque claro si una institución una entidad local en un momento dado no quiere saber nada con el gobierno no pondrá seguramente ninguna facilidad

es verdad lo que pasa es que el señor aldaiturriaga lo ha dicho

titánica yo era consciente de que traía una propuesta que efectivamente constituye un esfuerzo importante

es que no tenía sentido acordar algo que se iba a incumplir que no queríamos asistir a una sucesión de incumplimientos por una ley de cooperativas que en lo fundamental no cambia nada a pesar del tiempo transcurrido y así le dimos lectura pero ese no es el objeto del debate de hoy de manera que

todos los grupos han mostrado su acuerdo sobre el hecho de que la rehabilitación es un campo importante que se necesita por diferentes razones que aquí no da tiempo a explicarlas todas pero es verdad quedamos en que no se puede consumir el suelo que es un bien escaso de forma creciente y expansiva sin antes atender a las posibilidades que tiene el parque edificado que como ya se ha dicho es antiguo y tiene necesidades

mejorar la accesibilidad y favorecer que la accesibilidad a las

edificios residenciales no constituya un problema ni existan barreras arquitectónicas lo que nosotros tratábamos no sé si con éxito o no

es que de la misma manera que coincidimos en la necesidad de rehabilitar el parque de viviendas de la misma manera

que están desocupados que están en el paro desde hace mucho tiempo que proceden de un sector

y que necesitan realmente emplearse

recualificación o para trabajar en otras ramas de actividad por qué no poner todo eso digamos en un mismo propósito y llevar adelante

sobre cómo hacerlo pero entendemos que precisamente un gobierno nada menos que un gobierno

humanos tiene todo un acervo de conocimientos y toda una tradición y una experiencia justamente para liderar sí

como lo puede hacer en otros ámbitos de la acción política y no creo que ninguna administración sea

tenga por qué ser susceptible de pensar que le están no nosotros respetamos la autonomía municipal y respetamos lógicamente el acervo competencial de cada institución pero es un propósito que no trata ni mucho menos de orillar las competencias de nadie

forma a algo que claro que se viene haciendo pero queremos que tenga digamos una dimensión y una perspectiva mucho mayor

se encontrarán con el problema de que las empresas que pasan los presupuestos algunas vienen del campo de la rehabilitación y otras acaban de incorporar porque ven que hay un segmento donde pueden entrar a trabajar

es decir hay muchas situaciones yo no puedo describir todas y dar solución a todos los problemas lo que digo es si tenemos acuerdo en lo esencial

hombre no sería yo creo que en fin desafortunado tener un acuerdo de esta naturaleza aprovechar esta situación

ese impulso ese digamos ese crédito de que lleve adelante una operación de esta naturaleza pensamos que sería positivo y que todo esfuerzo
todo esfuerzo realizado en esta dirección no será en balde eskerrik asko itxaso jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea señor itxaso para nosotros no es lo mismo

la propuesta nuestra el parlamento vasco insta al gobierno vasco a colaborar con las restantes administraciones públicas en el fomento de la realización

y esto no ha sido aceptado por ustedes en fin para nosotros como digo las palabras tienen su importancia tienen sus implicaciones y su valor

la clave en esta materia a nuestro juicio es la financiación porque la posible

energética se basa fundamentalmente en el retorno económico derivado del ahorro energético la voluntad de rehabilitación de los particulares y del gobierno existe los mecanismos jurídicos pueden perfeccionarse pero ahí están pero lo que permitirá el éxito de la política rehabilitadora es que los agentes implicados singularmente repito las comunidades de propietarios

a los gastos que la realización conllevan porque si no hay obras que realizar no se crean empleo no se crean puestos de trabajo señor itxaso

un ente abstracto distinto de los propietarios de pisos que la forman esos propietarios algunos están en paro otros sufren ejecuciones hipotecarias y otros recortan gastos

y la subvención pública llega según la regulación actual hasta un máximo del cincuenta por ciento según los casos

cómo obtenerla ese es el reto al que debemos dedicarnos desde

sobre la coordinación en la ley vasca de vivienda decir algunas palabras porque tiene su importancia en la ley de vivienda recientemente aprobada por este parlamento

se mandata a las administraciones competentes y de manera especial a las entidades locales a impulsar el fomento

y lo es con tal fuerza que para actuar en esta materia se necesita una previa declaración municipal de estado de necesidad de rehabilitación o regeneración urbana

acompañada de una descripción de la solución técnica y de la valoración económica de cada uno de los inmuebles afectados para proceder a su rehabilitación y aun más la ordenación de las áreas de rehabilitación y regeneración urbana en el artículo cuarenta y tres

saben se realizan sin ninguna intervención del gobierno lo elaboran y aprueban los municipios de euskadi y aun más sigo la gestión de rehabilitación y de

normalmente un convenio entre los propietarios y el ayuntamiento con todo esto los proponentes pretenden que el gobierno elabore en doce meses un plan integral en fin sin comentario los proponentes desconocen las reglas de juego que ellos mismos han elaborado para regular esta materia señor itxaso el tratamiento de la rehabilitación y la regeneración

seguramente ha sido una oportunidad perdida el gobierno vasco está cumpliendo está utilizando las herramientas disponibles para abordar esta materia a lo mejor resulta que este parlamento es decir nosotros no estamos a la altura de las circunstancias

no está alineada con la directiva europea sobre eficiencia energética no hemos sido capaces de diseñar herramientas adecuadas para la consecución de esos objetivos y me gustaría traer a colación una acertadísima frase de un ilustre urbanista el profesor del ivap

de que nos apliquemos para sacar provecho de las desgracias inclusive de esta ley de vivienda y en eso estamos porque el plan integral de rehabilitación propuesto choca con las determinaciones establecidas por ustedes mismos en la ley de vivienda eskerrik asko

muy muy brevemente yo supongo que claro lo que decía el señor itxaso que

mientras que el señor barrio como era una

una proposición abocada al incumplimiento pues por eso no se votaba y parece que esta está totalmente abocada al cumplimiento yo creo

y también con conseguir incorporar al mercado laboral a los parados de larga duración en especial en el sector de la construcción pero se trata

que sean posibilistas es decir que sea posible llevarlas acabo porque hablar de ese plan puede quedar muy bien sobre el papel puede quedar muy bien pero si luego no puede tener cumplimiento

más que en el papel además de que en la transacción han aprovechado como siempre que el pisuerga pasa por valladolid para zumbarle a la reforma laboral

cualquier ocasión que si no es una ocasión perdida por todo ello vamos a votar en contra de la enmienda transaccional

sí gracias señora presidenta señorías presento en nombre del grupo popular esta proposición no de ley iniciativa que hace referencia
al capítulo sexto de la ley de política agraria y alimentaria aprobada

el veintitrés de diciembre de dos mil ocho casi siete años

sexto de esta ley que se refiere a los daños catastróficos y que contempla dos artículos el artículo ochenta y tres y el artículo ochenta y cuatro donde por una parte se enumera o se dice que se hará una declaración

que así se estime y quese reglamentará para ello y además el artículo ochenta y cuatro lo que viene a decir es que se creará

fondo que tendrá que tener una dotación económica que se acordará entre las administraciones

para su aplicación como les digo después de siete años de varias iniciativas en esta cámara estos artículos siguen sin desarrollarse hemos presentado esta iniciativa instando al gobierno a que lo haga parece que tiene voluntad la fecha

acordado es junio de dos mil dieciséis a través de las enmiendas que se han presentado unos pedían un año otros tres meses y hemos llegado a ese acuerdo después de siete años un mes más un mes menos tampoco sería lo importante lo importante es que de una vez por todas el gobierno cumpla

de composición nacionalista en el dos mil ocho que fue apoyado por el grupo popular porque se presentaron un número importante de enmiendas que fueron admitidas y que somos

colaboradores o copropietarios de esa ley también en alguna medida y por lo tanto una ley que se aprobó con el ánimo de cumplirse pero como decía hoy hay artículos que no se han desarrollado y

muy importante porque como ustedes también recordarán es raro

sea por inundaciones sea por granizadas u otros efectos meteorológicos adversos que perjudican y dañan los cultivos por lo tanto si en el dos mil ocho considerábamos que esta iniciativa

que se desarrolle que se reglamente y que esté lista para aplicarse en aquellos casos que así lo requiera en las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos

se ha aportado también otro artículo de la ley que no está recogido en la iniciativa original pero que puede ser complementario a este que hace referencia al capítulo quinto de la ley de política

que el gobierno debe de hacer para que los seguros se vayan aplicando en todas las

con las diputaciones que son quienes gestionan eso la verdad es que

del porcentaje de aseguramiento que tienen los distintos cultivos

aseguramiento de casi el cien por ciento hay otros cultivos que están en porcentajes muy bajos con lo cual hay un trabajo importantísimo por hacer y ese artículo o el cumplimiento de ese artículo también se ha trasladado a la enmienda de transacción que hemos firmado voy a pasar a leer la enmienda porque bueno la tienen ustedes pero

tampoco hay mucho más que añadir más que instar al cumplimiento de la ley y que esperemos que una vez por todas esta sea ya la definitiva iniciativa que presentamos y que

y décimos en la enmienda de transacción el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que junto con las diputaciones forales

antes del treinta y uno de junio de dos mil dieciséis tal y como se recoge en la ley diecisiete barra dos mil ocho de política agraria alimentaria

presupuestaria en el punto dos décimos que el parlamento vasco inste al gobierno vasco

junto con las diputaciones forales la contratación de diversos seguros agrarios que permitan aliviar los daños producidos en la actividad agraria por eventos impredecibles conforme a lo establecido en la ley

este es el acuerdo al que hemos llegado que creo que tendrá la unanimidad de la cámara y lo que nos queda es velar

los programas de ayuda pública en estas situaciones de catástrofes contribuyen también a la estabilidad de la renta del sector por lo tanto

de un fondo de catástrofes necesaria para el sector y nos parece importante no solo porque lo establece la ley nos parece importante

objetivamente una catástrofe para un productor agrícola

la considera legal y la compensación depende de una declaración global del daño objetivo que diluye en el marco global y en la que

como ya se ha citado la ley prevé el fondo de catástrofes con dotaciones presupuestarias

para la concesión de créditos extraordinarios dichas previsiones del sistema de gestión de este fondo debe regularse por el reglamento por lo tanto es necesario y se necesita un plan de ayudas para paliar daños

y este sistema de gestión requiere coordinar entre todas las instituciones saben que mi partido tiene un empeño especial en esta área creemos que la colaboración entre las distintas administraciones es la manera más eficaz de atender lo que los ciudadanos nos demandan por encima de cualquier pelea competencial en este caso

la diputación foral de álava ya solicitó al gobierno vasco

el fondo de catástrofes estamos de acuerdo que se debe trabajar conjuntamente esta colaboración se debe reflejar en articular

para la consecución de créditos extraordinarios de acuerdo con la distribución orgánica funcional y económica correspondiente a gestión

reclamamos una mesa política para abordar y desarrollar lo previsto en la ley de política agraria para estudiar las necesidades y coberturas del fondo

en nuestra comunidad autónoma y es necesario que esta previsión legal tenga un primer reflejo en una previsión presupuestaria cada año en la cobertura de fondo de catástrofes desde el ejecutivo vasco

la creación del fondo debe ser una herramienta y ayuda para el sector para poder articular un conjunto de medidas paliativas y reparadoras que sean adecuadas a la situación creada el fondo

a contribuir al restablecimiento de la normalización agraria en las zonas siniestradas y también a facilitar con rapidez y flexibilidad los gastos que se deriven de la reparación de los daños catastróficos producidos el desarrollo reglamentario de la ley debe establecer también los requisitos que deberán cumplir para poder ser beneficiarios del fondo de catástrofes que las explotaciones afectadas estén inscritas

y los bienes dañados estén localizados en el ámbito geográfico

para el grupo socialista es una prioridad seguir apoyando a las explotaciones agrarias ganaderas y forestales por eso queremos atenderlas cuando sufren un percance que todos consideremos catastrófico

y ese apoyo se debe reflejar en políticas de apoyo público al sector por parte de este gobierno en políticas que permitan a los agricultores ganaderos y forestales efectuar pagos compensatorios

el brote de una enfermedad animal o vegetal una infestación por plagas

un incidente medioambiental y todo ello sea una acusada

lo repetimos en cada debate sectorial que tenemos en esta cámara nunca podemos olvidar que en las explotaciones predominan las pequeñas

por lo tanto sabemos que cualquier catástrofe que pueda sufrir puede desencadenar una situación complicada en los resultados económicos

de su quehacer diario fenómenos imprevistos que van a provocar la obtención de menores rendimientos

y destrozos por los daños causados hoy motivo de gran importancia para que el sector pueda contar con este tipo de ayudas preservar el medio rural su población su actividad económica

fomento de la alimentación de cercanía y de la calidad todos somos conscientes de que la actividad agraria encuentra importantes dificultades

que tiene el sector misión económica y misión territorial que la sociedad demanda del sector primario por lo tanto

de nuestra comunidad en esta enmienda de transacción que hemos acordado y firmado compartimos la necesidad en la creación del fondo de catástrofes es más que una mera compensación invertimos en profesionalización el cierre de las explotaciones del sector pensando en numerosos jóvenes del sector primario vasco así como la posibilidad de ayudar a fomentar el relevo generacional en las explotaciones agrarias ganaderas y forestales

y porque además es un debate relativamente farragoso en cualquier caso sí quisiera recordar que en febrero del dos mil trece al poco de comenzar las sesiones plenarias de esta legislatura yo me estrené como parlamentario precisamente en este foro

que yo recordé pudo deberse a una visión conjunta del problema y posiblemente a una intermediación de san valentín que era una fecha que se celebraba en aquel entorno en estas fechas estamos todavía lejos de san valentín pero como el acuerdo es mayor es coral es unánime

en cualquier caso al asunto efectivamente los artículos ochenta y tres y ochenta y cuatro de la ley de política agraria y alimentaria prevén la declaración

y esa regulación no se ha hecho todavía lo que necesariamente no está bien aunque seamos honestos y atendamos a la verdad

se ha atendido esa catástrofe y ha habido fondos que cada año se presupuestan para posible eventualidad también y a falta de desarrollo

se debe probablemente no tanto a un impulso político del gobierno como que es necesario que lo hagan entre cuatro instituciones

el esfuerzo que se requiere no es multiplicado aritméticamente si lo hace uno sino geométricamente

que los nuevos equipos forales me parece que son más briosos con el asunto y hoy mismo en la comisión de política agraria precisamente se está tratando

que ese impulso político que hoy se está haciendo

lleve la agilidad burocrática necesaria en el gobierno para desarrollarla

el gobierno lo aprueba en función de una serie de índices y se pone en marcha y a partir de ahí hay beneficiarios pero los beneficiarios tienen que cumplir una serie de requisitos ser agricultor o agricultora a título principal salvo creo

y que el daño se haya producido en un cultivo que no esté no que no esté asegurado que no esté previsto en el plan de seguros por cierto

para volver a reclamar la competencia de seguros agrarios que nos gustaría para ir avanzando en el desarrollo del estatuto de autonomía bien

eso quiere decir que si el producto

aunque haya sido dañado no puede recibir dinero del fondo de catástrofes de ahí viene nuestra enmienda a la totalidad que ha sido recogido gracias a dios

solo los cultivos extensivos los cereales están cubiertos en un noventa y nueve por ciento saben en cuánto está cubierto el cultivo más importante de toda la rioja alavesa el viñedo está cubierto solo en un veintisiete por ciento asegurado

tiene un seguro y el resto no lo tiene pero tampoco puede acudir al fondo de catástrofes por eso lo fundamental es que trabajemos para que el agricultor integre en los costos de explotación

es eso lo que hemos pretendido con esta enmienda transaccional por un lado que se regule el fondo de catástrofes y por otro que se incentive el seguro agrario por parte de los agricultores para terminar porque no da de más el tema

que dijo mientras vamos en pos de lo incierto perdemos lo seguro y es que creo

y lo que hoy nos concita aquí y por lo que tenemos que trabajar nosotros y las instituciones de gobierno y forales es para que se abandone tal camino